pero no se trata de consolar a los

se trata de responder a esos miles de ciudadanas y ciudadanos que los podríamos denominar

o pago lo que me piden o comen mis hijos egoera horretan gaude eaen hogeita bat mendean

lo primero decir la verdad como la estamos diciendo permanentemente no hemos pretendido ocultar la realidad se lo he dicho con los datos

de gasto operativo del año dos mil doce inclusive y también ahora voy a ser muy claro con ustedes la semana pasada escuchamos un ofrecimiento por parte de eh bildu en el pleno de política general

creo en la estabilidad y creo en los acuerdos podemos compartir la prioridad social para el presupuesto y hoy quiero dar un paso más nuestro compromiso es que los servicios esenciales

educación y protección social sigan siendo públicos y universales nuestro compromiso es mantener la plantilla estructural de estos servicios utilizando al máximo las posibilidades de reposición

mantener la prioridad presupuestaria para sanidad educación y protección social para el próximo año dos mil quince errealismoa eta egia bermatu ditut bi gauzak

conoce las cuentas económicas del gobierno y va a conocer también el techo de gasto para el año dos mil quince este año el déficit aprobado es el uno por ciento y esto es lo que tenemos que cumplir el próximo año será

pues esto es lo que tenemos que cumplir y no por deseo de este gobierno

es decir el próximo año tres décimas menos lo que significa doscientos millónes menos de capacidad de gasto sabe que tenemos que destinar

este compromiso con la reducción del déficit y la amortización de la deuda

incluso por las instituciones que gobierna también bildu estas son las cuentas reales el presupuesto dependerá por lo tanto de la evolución de la economía

conocerá esta información de primera mano yo lo que hago es reiterar nuestro compromiso con un presupuesto social estamos dispuestos a mantener la dotación en sanidad educación y protección social reitero que vamos a mantener el empleo público

y social para alcanzar un acuerdo lo dije en el pleno de debate de política general la clave para crecer

es la estabilidad esta semana hemos conocido el primer crecimiento interanual del empleo desde dos mil ocho y creo que es el momento por lo tanto de remar juntos remar juntos ahora significa más crecimiento y más oportunidades de empleo esto es lo que yo creo que el país necesita y este es el objetivo

ustedes hicieron un ofrecimiento y hoy lo ha reiterado usted que y considero sincero si lo mantienen podemos llegar a un acuerdo hori da gure plataforma errealista eta gardena adostasuna lortzeko osoko bilkuran esan nuen

egonkortasuna zertarako señor urruzuno usted reitera

recortes es una cuestión que a mí me preocupa sobremanera este concepto de recortes

a las dificultades que atraviesan muchas personas en euskadi

muchas familias por los efectos de una profunda crisis que dura ya más de un lustro y precisamente por esta sensibilidad le reitero que nuestro compromiso prioritario es el mantenimiento y garantía de las políticas sociales a pesar de las dificultades económicas le he dicho en mi primera intervención

constatable en los presupuestos aprobados este año dos mil catorce y este es un compromiso que también mantenemos para el próximo ejercicio dos mil quince se lo puedo garantizar porque esta es nuestra prioridad es el foco de nuestro presupuesto y es donde tenemos claro que no podemos fallar y no vamos a fallar el gobierno vasco en ese concepto de recortes no está recortando en las políticas sociales no en las políticas sociales

el mantenimiento de las políticas sociales está recortando la capacidad de inversión y de esfuerzo en otras materias que también son fundamentales para el país y lo asumimos

lo asumimos por mantener una educación pública y universal lo asumimos por mantener un sistema social que garantiza la cohesión

por mantener esas políticas a las que no aplicamos recortes hemos tenido que adecuar nuestros presupuestos en otros campos contamos con menos recursos que hace dos años y tenemos más compromisos financieros esos que sí tenemos que cumplir

mantener el presupuesto social en tres departamentos ha requerido importantes sacrificios

así de claro concepto de recortes aplicado a qué con menos ingresos con menos recursos con menos presupuesto de gasto operativo a qué aplicamos los recortes si es valido ese concepto de recorte con menos recursos

y no siendo a las políticas sociales es gracias al sacrificio del resto de consejeros y consejeras del gobierno vasco porque estamos dando prioridad al gasto social el presupuesto en el departamento de empleo y políticas sociales se ha incrementado incrementado en ciento ochenta y tres millónes

incrementado en casi cien millónes el de educación incrementado en casi ciento treinta millónes nadie en euskadi ni siquiera usted duda de que vamos a seguir garantizando una educación pública una sanidad pública y un sistema público de protección social señor urruzuno

lehendakari el veintidós de septiembre

una comunicación masiva e indiscriminada y sin acuse de recibo

de forma indebida es de destacar que en la comunicación la administración ofrecía como único cauce de consulta

los socialistas somos los primeros en defender la eficacia en la gestión de los recursos públicos

llegue al destino para el que se ha previsto el desembolso pero la carga de la prueba ante deficiencias de la gestión

está en la administración es a lanbide a quién corresponde escrutar primero cada uno de los euros pagados y establecer después los mecanismos de comunicación con los administrados

que son por definición personas en riesgo de exclusión social la forma de comunicar y la elección del momento cuando algunos

sobre supuestos falsos nos parece de un oportunismo por parte del gobierno vasco

la idea perversa de que existe un fraude social generalizado queremos saber si el lehendakari
que en teoría defiende el sistema de la renta de garantía de ingresos comparte esta manera de dirigirse a quienes menos tienen y más necesitan eskerrik asko

señora sarasua mire la carta dice lanbide servicio vasco de empleo dentro de su competencia de gestionar el régimen económico de las prestaciones ha detectado la existencia de una cantidad indebidamente recibida en relación con la renta de garantía de ingresos o con la prestación complementaria de vivienda

con los datos que aparecen en el siguiente cuadro esta comunicación posibilita el pago voluntario antes del inicio de la instrucción del procedimiento de reintegro esto es importante antes del inicio

y se explican cuales son las opciones si no está de acuerdo no debe realizar nada en espera de que se inicie insisto otra vez de que se inicie el procedimiento de reintegro únicamente se atenderán consultas

electrónico la comunicación que enviamos

no incumple ninguna forma de notificación de la administración porque no es una notificación es una comunicación de carácter meramente informativo como ha reconocido el ararteko

ante la primera de las consultas que se le han formulado

no se hace sentir a nadie como un defraudador se le comunica cuál es su situación con respecto a lanbide y la forma de solucionarlo mediante un procedimiento voluntario así como de las

luego en la interpelación de upyd daré más datos que ahora no puedo por falta de tiempo pero señora sarasua

cuando en diciembre del año dos mil diez el gobierno anterior comunicó que se iban a suspender que se iban a suspender

en virtud de unos cruces de datos informáticos que no eran correctos

tuvimos que parar eran también defraudadores entonces no le preocupaba esto yo lo recuerdo bien muy bien

señor consejero le recuerdo que lanbide se hace cargo de las prestaciones de la renta de garantía de ingresos desde el dos mil doce

esta atribución de las prestaciones sociales al servicio de empleo no ha sido cuestionada por el actual gobierno señor consejero usted sabe muy bien que la puesta en marcha de lanbide no fue tranquila y que también existen posibles cobros indebidos desde el dos mil once imputables a las diputaciones forales

encontrará en cualquier hemeroteca aquellos expedientes enjaulados de la diputación

aquellos que no llegaban a las oficinas de lanbide con la excusa de que estaban recurridos y que el gobierno si quería los buscará a través de los sistemas informáticos pero esto poco importa a las diez mil personas a las que se les reclama las cantidades por cobro que ellos nos solicitaron que se debieron a las deficiencias de gestión

y a la falta de interconexión y de comunicación bajo la excusa de una u otra competencia el hecho es que la administración reclama cantidades que en este momento muchas personas

les piden a herederos de personas fallecidas y se les pide a quienes a duras penas cubren sus gastos más perentorios esto que se hace conscientemente con los más

no conocemos envíos masivos de comunicaciones para reclamar este dinero defraudado fiscalmente sin embargo esas diez mil personas que no han defraudado se les hace sentir como delincuentes

porque entiendo que así se lo habrán comunicado desde la dirección de lanbide que lo aplicativo informático no permite especificar los motivos concretos

tan solo indican la cantidad a devolver y las opciones de la cancelación de la deuda la solución de lanbide para buscar la eficacia

a quienes más sufren hoy en euskadi ha sido un despropósito que deben corregir pidiendo a la vez excusas los socialistas pedimos al gobierno vasco que se analice

los efectos que implica la devolución de la deuda en concepto de prestaciones indebidas

la devolución de las cantidades o de suspender el pago hasta un mejor momento eskerrik asko sarasua andrea erantzuteko aburto jauna zurea da hitza

hay cobros en la época de las diputaciones de hecho se siguen ingresando a día de hoy de las tres diputaciones

cantidades a las personas que han sido perceptoras de rgi tratamos de ser claros sin apremiar a nadie ofreciendo alternativas bien para informarse bien para regular su situación entendemos que haya quien se haya alarmado y pensamos que tal vez sin ninguna duda podríamos haber evitado las aglomeraciones habiendo hecho un envío de cartas en varias fases

elementos también lo hemos hecho de manera con algunos defectos en la implantación de un sistema de atención telefónica pero lo importante es que podemos empezar a revertir la situación

en los estatutos de lanbide en su constitución no se dotó ni del personal ni del procedimiento ni de las aplicaciones informáticas y yo sé que hubo dificultades y la sigue habiendo a día de hoy

lo hacemos con responsabilidad sin estigmatizar a nadie legitimando el sistema demostrando

pero sobre todo al sistema de protección social entre todos queremos defender eskerrik asko aburto jauna gai zerrendako hamahirugarren puntua galdera

gracias presidenta señor lehendakari hace casi medio año desde que su gobierno y las diputaciones acordaron aplicar un plan de lucha contra el fraude fiscal pero hasta la fecha desconocemos cuáles han sido los resultados creemos que pudo y debió hablar de ello en el debate política general pero no lo hizo

como la evolución de los recursos que necesitamos para llevar a cabo verdaderas políticas de recuperación económica y de sostenimiento de los servicios públicos y de las políticas sociales

o simplemente es que por lo hecho hasta ahora tenía poco que informar y muy pocas medallas que ponerse sea por lo que sea a los socialistas nos ha quedado la preocupación

miles de millónes de euros y esta preocupación es todavía mayor teniendo en cuenta que dentro de unos días se va a reunir el consejo vasco de finanzas

y que servirán de base para elaborar los futuros presupuestos del gobierno y de las diputaciones forales y por eso señor lehendakari le preguntamos qué objetivos de ingresos

en esa próxima reunión del consejo vasco de finanzas eskerrik asko pastor jauna erantzuteko jaurlaritzaren ordezkaria den gatzagaetxebarria jaunak dauka hitza

bien gracias señor consejero pero en fin

contra el fraude fiscal porque mientras tanto ustedes siguen instalados en ese viejo discurso

el gobierno gasta lo que puede el gobierno tiene que ajustarse a las disponibilidades presupuestarias somos conscientes nos decía el lehendakari en el pleno de política general que vivimos momentos de mayor demanda de servicios públicos y sociales

y nos preocupa créame que mucho esa insistencia suya en la ausencia de dinero para hacer políticas de bienestar sin que nos aclare cómo recuperar

que suponen el fraude todos los años y eso tenemos que conocerlo ya a la mayor brevedad

y se han fijado las diputaciones forales de recuperación de dinero proveniente del fraude fiscal

tiene derecho a saber cómo funciona ese plan de lucha contra el fraude que usted tiene comprometido con nosotros las previsiones de ingresos por la parte fiscal entendemos que tendrán barrera de medición objetiva pero hay una parte importante que supone ingresos adicionales extraordinarios y muy necesarios y para los que no sabemos qué es lo que se está haciendo

plantea exactamente como objetivos a cubrir y a este país le va en ello su futuro qué número de defraudadores se han detectado qué cantidades se han podido recuperar qué se ha hecho con medidas de control como las interconexiones informáticas previstas qué objetivos antifraude tienen previstos para el próximo año porque

y luchar contra el fraude no es presumir como ha hecho un diputado general de que se conoce a muchos defraudadores con fajos de billetes luchar contra el fraude significa investigarlos perseguirlos

como no han dicho nada cuando una diputación la de álava se descuelga del acuerdo fiscal con el gobierno a los dos días de firmarlo y la respuesta es

o cuando una consejera de su gobierno la señora tapia utiliza la política fiscal para meter miedo a los empresarios e indisponer a gipuzkoa con el resto de euskadi

nos está preparando para una nueva política de recortes sociales porque pensamos que ustedes ya saben que a esas alturas con ese criterio no van a poder contar con nosotros

sí gracias presidenta buenos días señor lehendakari bajo a hablar de las víctimas del terrorismo bajo a hablar de justicia de verdad y de memoria bajo a reivindicar justicia verdad y memoria no quiero hablar de otras cosas hay otros puntos en orden del día y otros momentos para hablar de otros temas yo quiero hablar específicamente de esto y creo que el asunto que le planteo es muy concreto

si piensa el gobierno vasco impulsar la colocación de hitos y placas conmemorativas y de homenaje en todos los lugares de la geografía vasca donde fueron asesinadas

la pregunta por lo tanto es muy concreta creo que este no se puede considerar como un asunto puramente municipal es algo más y por eso preguntamos

en junio presentamos el documento que se titula culminando el mapa de la memoria sugerencias para desarrollar

actuaciones de memoria y reconocimiento a las víctimas del terrorismo y la violencia lo hemos remitido a eudel y a todos los ayuntamientos de euskadi el documento no impone no nos corresponde a nosotros como gobierno señor maneiro

lo siguiente promover el diez de noviembre la conmemoración institucional del día de la memoria en cada municipio

se sugiere comenzar por un acto institucional de memoria personalizado con cada víctima coincidiendo con la fecha del asesinato

se sugiere crear un referente memorial de consenso se recomienda que en este espacio queden inscritos los nombres de las víctimas a las que se recuerda

de placas siempre que haya consenso con las familias señor maneiro y entre los partidos representados en el municipio y esta es una cuestión seria

no quieren y si los ayuntamientos se niegan qué va a hacer el gobierno nada únicamente recomiendan únicamente sugieren este no es un asunto puramente municipal debería ser prioritario para el gobierno

debería asegurar la instauración de esas placas en todos los lugares donde fueron asesinadas víctimas del terrorismo tiene que comprometerse a ello

hay muchísimos ayuntamientos que se han negado a hacerlo y que se van a negar en el futuro y el gobierno por lo tanto no puede permitir eso tiene que tomar cartas en el asunto así debería ser efectivamente así debería ser ustedes no quieren

es obligación del gobierno obligar a los ayuntamientos y si no hacerlo el propio gobierno la instauración de placas conmemorativas para todas las víctimas del terrorismo y yo le pido un compromiso sincero aquí y ahora para que en el menor tiempo posible en todos aquellos lugares donde fueron asesinados víctimas del terrorismo se coloque una placa

recuerdo y homenaje quiero que usted se comprometa se compromete señor lehendakari o únicamente sugiere o únicamente ya digo esto no es un asunto puramente municipal si no lo hacen los ayuntamientos debe hacerlo el gobierno las víctimas del terrorismo se lo merecen la sociedad vasca democrática se lo merece en fin tal como

recientemente se trata de que la desidia de las instituciones no borre la historia se trata en este caso de que la desidia del gobierno vasco la desidia del lehendakari no borre la historia ni la verdad de los hechos ocurridos

eskerrik asko legebiltzarburu andrea señor maneiro me lo ha dicho usted en su primera intervención esta mañana yo le digo

sea demócrata señor maneiro sea usted demócrata dónde queda para usted la autonomía municipal dónde quedan para usted las competencias municipales

y yo le pregunto y si las familias se niegan qué hace el gobierno imponerles a las familias

la palabra respeto tiene mucha importancia respeto a la autonomía municipal a la voluntad de las familias porque usted

de que hay familias que prefieren que no haya placa o que figure el nombre de su familiar las hay señor maneiro este gobierno impulsa el mapa de la memoria con convicción plena una política de memoria conlleva

y de humanidad también una afirmación de los valores democráticos y una pedagogía de deslegitimación social de cualquier agresión a los derechos humanos

de paz y convivencia pero tampoco nos vamos a precipitar tenemos que avanzar desde el consenso y la asunción de unos valores que consoliden definitiva y una convivencia para toda la sociedad está dispuesto usted a ese consenso señor maneiro eskerrik asko

gracias presidenta el señor camino y el señor nieves han sido finalmente imputados

en la empresa pública ibarzaharra han sido imputados por fraude y malversación el señor iñigo camino desempeñó el cargo

y septiembre de dos mil nueve el señor nieves desempeñó este cargo entre febrero de dos mil once y el treinta de enero de este mismo año se habla de una relación laboral simulada

sin trabajar el informe de la inspección de trabajo constata el carácter fraudulento del empleo en una empresa pública de los dos destacados miembros de otra vez el partido nacionalista vasco qué opinión le merecen las imputaciones habidas en la empresa pública

kudeatzailearen albokoa y tal como queda establecido en el acuerdo la gestión dirección técnica y administrativa de la sociedad queda atribuida a la figura del gerente únicamente él don salvador galarraga ha sido el máximo responsable de ibarzaharra hasta la rescisión de su contrato el veintisiete de enero de dos mil catorce

el señor camino es nombrado adjunto a la gerencia de ibarzaharra

y su trabajo está orientado a la promoción en medios de la comunicación y la comunicación de la sociedad ibarzaharra y el señor camino cesa de manera voluntaria el treinta y uno de agosto de dos mil nueve

acordó la contratación de don juan cruz nieves como adjunto a gerente de la sociedad en este caso por su probada experiencia en materia urbanística con el fin de apoyar al gerente

o de otro tipo de incidentes ni por el gerente máximo responsable ni por el consejo de administración sobre la figura del adjunto a la gerencia ni en uno ni en otro caso

de dos mil trece como usted ha dicho se presenta una denuncia ante la inspección de trabajo

a día de hoy solamente el gobierno vasco tiene que hacer dos consideraciones una máximo respeto al procedimiento judicial que está abierto y al mismo tiempo

respecto a la presunción de inocencia de esas dos personas imputadas eskerrik asko tapia andrea maneiro jauna zurea da hitza

sí gracias señora consejera efectivamente como ha señalado ibarzaharra es una empresa pública participada por el gobierno de españa

y por el ayuntamiento de sestao por lo que concluimos que efectivamente todas estas instituciones debían y deben estar en el ajo y la inspección de trabajo a constatado

del empleo en ibarzaharra de los dos destacados miembros del partido nacionalista vasco estos son hechos extraordinariamente graves nosotros lo hemos traído aquí a este parlamento hemos presentado interpelación al gobierno pregunta oral

se negaron a comparecer y los que comparecieron prácticamente no aportaron nada

diciendo que ellos no sabían nada de las decisiones tomadas en ibarzaharra

ni el gobierno de españa efectivamente tampoco ni la diputación foral

ni tampoco el gobierno vasco nadie sabía nada de lo que se estaba haciendo

quién pagaba las nóminas quién firmaba las nóminas el consejo de administración qué hacían los miembros del consejo de administración en representación del gobierno vasco nadie sabía nada

a parte de esas dos valoraciones que ha realizado presunción de inocencia y respeto a las decisiones judiciales no le da qué pensar

esto que haya dos altos cargos del partido nacionalista vasco supuestamente hay una denuncia y la inspección de trabajo lo dice que cobraban dinero público sin ir a trabajar esto señor lehendakari cómo se llama esto qué es esto es mala gestión

corruptelas esto es corrupción qué es esto quizás efectivamente haya que esperar

algo más puede decirse porque aquí el grupo parlamentario del partido nacionalista vasco ha justificado estas actuaciones que estas personas son absolutamente inocentes y que efectivamente iban a trabajar y cumplían su trabajo esto es lo que dijeron es decir que parece que el grupo nacionalistas sí sabía o decía que sabía que cumplían sus funciones en fin

esto como se llama fraude corruptela o corrupción eskerrik asko maneiro jauna erantzuteko tapia andrea zurea da hitza

respeta a todos los poderes respetemos lo que vaya a decir el juez en este caso

ha hecho mención al consejo de administración no es el grupo nacionalista el que lo dice lo dice el consejo de administración leo literal cinco de mayo de dos mil once

el gerente el consejo toma razón de que el adjunto al gerente de la compañía continua desempeñando las funciones encomendadas de gestión y representación literal consejo de administración veinte de octubre del dos mil once literal para comentar que la estructura del personal de la compañía funciona con normalidad particularmente el adjunto al gerente continúa desarrollando las funciones que recoge su relación laboral con su compañía no requiriendo las mismas tareas presenciales en las oficinas por el momento

sigo diecinueve de diciembre de dos mil once consejo de administración el gerente de la sociedad expone al consejo que el adjunto al gerente reporta a la sociedad con una periodicidad semanal asistiendo a todas las reuniones a las que es convocado y participando activamente al funcionamiento de la sociedad para no haber trabajado nunca en la sociedad parece que no es un mal récord reportar semanalmente y en tres consejos de administración literalmente queda recogida así por tanto

vamos a ver qué es lo que ocurre vamos a respetarlo eskerrik asko tapia anderea gai zerrendako hamaseigarren puntua

gracias señora presidenta señora consejera es conocida la situación que el sector de leche de la comunidad autónoma vasca especialmente el de ovino sufre la situación que está sufriendo por los impagos de la empresa aldanondo esta empresa tiene por costumbre efectuar los pagos de leche que recoge a los ganaderos con retraso

y es por lo que le preguntamos cuáles son los criterios del gobierno para evitar y mitigar esta penosa situación en el sector ovino de leche especialmente

tuvimos ocasión el pasado lunes de comentar especialmente la situación de esta empresa en comisión pero sí me gustaría señalar unos aspectos adicionales

si bien es cierto que hay empresas que por su condición detractoras del sector primario como es en este caso aldanondo merecen una consideración especial por supuesto

una de las que sería registradas dentro de la denominación de origen idiazabal que como usted sabe tiene ciento veintitrés en sus registros

según los datos de los que disponemos en estos momentos aldanondo recoge aproximadamente un diez por ciento de todos los litros de leche de ovino inscritos

ante una empresa en dificultades es cierto que no ha podido pagar a sus proveedores que lo lleva haciendo con retraso y es una situación muy delicada por supuesto que sí pero no podemos poner en cuestión como consecuencia de esto ni debemos extrapolar

al conjunto de la situación del ovino de leche en euskadi lo comentamos en la comisión estamos abordando distintas actuaciones para conseguir que esta empresa pueda ser reflotada y funcione

se refiere a este hecho en concreto y no al conjunto del sector en este momento existe una gran demanda del queso idiazabal en el mercado

lo que nos hace ser optimistas en cuanto a la continuación del sector además desde primeros de año estamos trabajando dentro de la quinientoso idiazabal gobierno vasco junto con el gobierno de navarra

una estrategia común basado en el aumento y el mantenimiento del número de queserías de producción artesanal pero también teniendo en cuenta los intermedios y las grandes empresas productoras que hacen que otras ganaderías único objetivo es la producción de leche y que desde luego se encuentra en una situación de una cierta incertidumbre puedan tener una seguridad de venta

tenga dónde vender su leche y como continuar la producción de una forma eficiente responsable y ofrecer una garantía de salida a todo el sector

señora consejera usted sabe y conoce que hablamos de una empresa agroalimentaria que tiene

ortodoxa ya fue sancionada en dos mil ocho por falsificar etiquetas de denominación de origen idiazabal a la vez que era subvencionada por el gobierno vasco con

desproporcionada para la actividad que estaba desarrollando y que desarrolla anticipo del que solo ha devuelto

dos millónes novecientos diez mil euros y ya veremos como cumple con sus obligaciones empresa aldanondo que

ha venido retrasando en los pagos reiteradamente pero lo que eran retrasos antes hoy son impagos

y desconocemos el número de explotaciones concretas pero sí tenemos claro desde el grupo popular que esto supone una importante quiebra para el sector ovino

es una cantidad importante repartida en explotaciones por lo tanto

extrema creemos que esto perjudica y ha perjudicado a muchas explotaciones y usted estará conmigo que estos hechos desmotivan

con aquellas expectativas que algunos jóvenes podían tener en continuar con las explotaciones

nos gustaría saber señora consejera qué están haciendo ustedes para que se generalice el contrato en el sector lácteo de nuestra comunidad autónoma y especialmente en el sector ovino si están trabajando en ello

con el fin de proteger sus intereses ante la industria agroalimentaria existe algo más que la denominación de origen

por lo tanto me parece muy bien el enfoque que dan a la denominación de origen pero piensen en alternativas no es la única alternativa

creemos que hay otras alternativas qué están haciendo para evitar que estos ganaderos sigan acumulando perdidas entramos otra vez en la campaña de leche dos mil catorce dos mil quince esas explotaciones están pensando en ellas qué están haciendo ustedes tienen ya el registro de productores y empresas que recogen desde el año dos mil trece es obligatorio por lo tanto tienen los datos exactos

registros y me gustaría saber que están pensando para que estos ganaderos no sigan acumulando pérdidas por lo tanto señora consejera creemos que

para hacer complementarias para evitar esta situación y qué va a pasar con ese dinero que se les debe a estos ganaderos qué están negociando

de quiebra qué alternativas están pensando para que esos ganaderos de alguna forma recuperen ese capital

en primer lugar la empresa aldanondo es una empresa en dificultades por tanto estamos trabajando para que esa empresa no entre en concurso de acreedores consigamos darle viabilidad a través de nuevas inversiones a través de nuevos inversores privados que permitan

continúe siendo viable continúe dando salida a esa cantidad de ganaderos que como bien decía usted no están teniendo relevo generacional por esa situación de incertidumbre la parte al desarrollo empresarial que seguimos creyendo que es una parte importante y como bien dice la empresa aldanondo puede dirigirse a lo que es producción de quesos

consideramos que ese tipo de empresas es importante y en segundo lugar qué vamos a hacer para que estos impagados sigan cobrando evidentemente si la empresa es viable y conseguimos que así lo sea conseguirán cobrar porque ese es el objetivo primordial pero este año

si se produce algún problema pueda derivarse a otras queserías o a otras empresas que necesitan de esa leche para poder continuar con su producción tenga usted en cuenta que estamos trabajando en los dos ámbitos en la parte de la continuación de la industria la continuidad y en la parte de los proveedores que en este momento

horregatik galdetzen dizugu vais a mantener

de la ley de actividad comercial unos criterios para declarar zonas interés turístico y por tanto permitir la liberalización de horarios unos criterios tan amplios que en la práctica van a permitir que por la puerta trasera y con la excusa del turismo

de horarios en el comercio en prácticamente la totalidad de la comunidad eskerrik asko casanova jauna

sektorearekin dagoeneko martxan dugun anteproyecto de ley de la cuarta modificación de la ley de actividad comercial

ante la situación que se nos ha sobrevenido por la ley del estado la viceconsejera del ramo emitió

una resolución por la cual en bilbao concretamente se limitaba la plena a unas zonas determinadas y a unos ámbitos determinados creemos que esa es la forma de trabajar limitando y trabajando con el sector porque se ha hecho de la mano del sector

el trabajar el fortalecimiento de la actividad comercial y continuar como hasta ahora trabajando de la mano del sector y de la mano de los implicados los municipios de nuestro territorio

sí gracias presidenta señor consejero lanbide ha remitido en las últimas semanas cartas informativas

perceptores de la renta de garantía y de la prestación complementaria de vivienda en las que

que supuestamente se les han estado pagando erróneamente en total son unos cincuenta y seis millónes de euros los que reclama lanbide creo que

que se ha producido en lanbide desde que el gobierno anterior hacerse cargo de la tramitación de las prestaciones económicas de estas prestaciones sociales demuestra que ha habido una mala gestión evidente en este asunto y que por lo tanto puesto que ha habido una mala gestión debe haber también una serie de responsables de esa mala gestión en la actualidad hay más de sesenta y cinco mil perceptores de la renta de garantía de ingresos por lo que

en las que se les reclama cantidades pagadas de forma indebida supone que afecta

es decir a más del quince por ciento de los perceptores de la renta se les calculó mal sus prestaciones

esas prestaciones es una cantidad altísima de errores que demuestra ya digo que ha habido mala gestión esta situación ha provocado una profunda preocupación entre esas miles de personas que han recibido esas cartas muchas

a las oficinas de lanbide para pedir explicaciones hasta el punto también de colapsar en algunos momentos las centralitas y las propias oficinas sin obtener respuestas satisfactorias usted ya reconoció unos meses que se habían producido una serie de errores calificándolos de cobros indebidos aunque yo creo que es más bien pagos indebidos aunque no aclaró debían exclusivamente al incorrecto proceder de lanbide y mucho menos comunicó a este parlamento que fuera intención de lanbide dirigirse a esas diez mil personas para pedirles el reingreso de esas cantidades económicas

ahora con la reclamación de devolución sería muy grave evidentemente para la mayoría de esas personas cuyos únicos ingresos son precisamente esas ayudas sociales en el mejor de los casos son personas con escasos recursos se imagina señor consejero el impacto que tuvo que representar

recibir una carta de la administración en la que se exige la devolución

tres mil quinientos euros o mil quinientos se puede hacer usted

miles de familias que veían que de repente sus muy escasos ingresos se iban a ver reducidos aún más por unos errores en ningún caso achacables a ellas

si puede en su lugar y saque conclusiones usted que siempre hace gala

a los problemas sociales parece que detrás de todo esto está el colapso que se produjo al asumir el gobierno la tramitación de estas prestaciones sociales que hasta entonces llevaban a cabo los ayuntamientos el colapso fue tal que al parecer se dio

de aligerar las tramitaciones con lo que muchas solicitudes no se revisaron correctamente o no se calcularon bien en fin una chapuza monumental

sin saberlo y no parece de recibo que meses o años después se les pida que devuelvan

y sin mayores explicaciones lo cobrado de más por un error de la administración y si esto se decide que sea así en nuestra opinión la administración lo que tiene que hacer el gobierno y usted mismo es asumir los errores que se hayan podido cometer y en todo caso explicar la situación a la ciudadanía para que tenga claro la ciudadanía qué es lo que ha ocurrido y qué es lo que va a ocurrir a partir de ahora

para esas personas para esas familias supone desestabilizar más

ya de por sí difícil porque tener que vivir de las ayudas sociales no es plato de buen gusto para casi nadie porque la mayoría de nuestros conciudadanos lo que quisiera es tener un puesto de trabajo y vivir de él no depender de esas ayudas

días declaraciones públicas que nosotros consideramos perfectamente comprensibles había quien decía que o pago lo que me piden o comen mis hijos y

que pague quien se haya equivocado y dimita el responsable

en fin son opiniones que yo considero bastante razonables o en todo caso entendibles dada la situación de estas personas si esta situación se ha detectado habría también que preguntarse cuántos expedientes erróneos se han tramitado pero en sentido contrario es decir personas que hayan cobrado menos de lo que les correspondía o incluso que se les haya denegado de forma errónea el derecho a la prestación señor aburto

y qué se ha hecho con ellos se les ha pagado la diferencia si en el fondo este asunto es un escándalo por ser una chapuza monumental una muestra del mal funcionamiento de lanbide en los últimos tiempos en la forma también lo es pensamos que se han cometido errores las cartas enviadas no pueden considerarse un requerimiento formal de devolución

ni en la misma se alude a ninguna infracción concreta ni alude

la supuesta infracción es decir sin invalidas legalmente aunque usted

a una pregunta anterior decía que eran simplemente cartas comunicativas además

el pago indebido ni si hay opciones a hacer alegaciones o recursos es decir hay miles de personas que están en esta situación muy preocupadas por lo que puede ocurrir qué les puede ocurrir

estaríamos ante un fallo de la gestión

a todos estos hechos pensamos que el gobierno debe explicar perfectamente bien qué ha ocurrido ha procedido hasta ahora y cómo va a proceder en el futuro cómo por cierto también van a poder devolver estas personas las cantidades abonadas

en qué plazo o si van a poder recurrir creo que son respuestas que muchos ciudadanos están esperando y en todo caso

quién ha montado este lío quién es el responsable de esta mala gestión de estos errores acumulados durante los últimos años nada más y gracias

escándalo chapuza monumental se dice yo son frases gruesas que pueden quedar bien ante la ciudadanía pero que a mi modo de ver no tienen la seriedad requerida para un debate de este tipo

y también por la rotundidad de sus manifestaciones dice en la justificación de su interpelación una cosa que no es cierta y a partir de ahí construye un argumento para concluir que es lanbide quién comete errores porque en ningún caso dice usted esos errores son achacables a las personas preceptoras

entiendo que en todos los casos según usted son achacables a lanbide señor maneiro

que yo reconociera que se habían producido errores y que los califiqué como cobros indebidos se cometen errores en la tramitación administrativa pero los cobros indebidos son otra cosa errores cobros indebidos pagos indebidos se cometen errores porque los programas informáticos no son perfectos porque

y porque ninguno de quienes tenemos la responsabilidad de gestionar todo esto

somos infalibles leíamos el otro día que una de las cartas llegó a una persona que ya había fallecido

que no figuraba como tal en nuestros archivos informáticos

un error y es posible que haya más y por eso traslado mis disculpas públicas en todos y cada uno de los casos en los que nos hayamos equivocado pondremos todo nuestro empeño en que no ocurran

de ejercer nuestra responsabilidad señor maneiro también sentimos que la recepción de la carta haya causado preocupación en muchas personas

sin conseguirlo por la acumulación de llamadas y personas he reconocido antes y lo hago nuevamente no hemos acertado con la atención telefónica

tratamos de informar de la situación de forma personalizada sin apremios ofreciendo alternativas bien para informarse o bien para regular su situación pero entendemos también que haya quién no interprete de esa manera el contenido del texto y se apresure

tal vez podríamos haber evitado las aglomeraciones registradas

y en la central telefónica habiendo hecho un envío de cartas en varias fases y no todas a la vez con respecto al fondo de la cuestión señor maneiro hace usted una descripción falsa de la realidad

y luego reclama la devolución de cantidades a personas que en ningún caso son responsables de nada

los cobros indebidos no son errores puede que una parte lo sean por responsabilidad de lanbide o de las propias personas perceptoras pero lo cierto

de los cobros indebidos se generan cuando por diferentes causas hay una modificación de las condiciones originales de la persona

no tiene conocimiento de la misma en el momento en que se produce cuáles son esas condiciones por ejemplo cambios en el número de miembros de la unidad familiar o la realización de trabajos esporádicos que no se comunican a lanbide

y también pasará que en algunas ocasiones a pesar de que se hayan comunicado no se han recogido correctamente pasará en alguna de las ocasiones

de comunicar estas circunstancias a lanbide luego no puedo aceptar como he dicho antes que nos encontremos ante un error generalizado no comunicar a lanbide esos cambios es fraude

pero yo en ningún caso me atrevería a llamarlo fraude generalizado

aunque no niego que haya casos ya lo he hecho en los que nos hemos equivocado sin ninguna duda

que genera pagos indebidos y que no es achacable ni a lanbide ni a los perceptores

de cada mes días posteriores hasta el final de mes esa persona puede trabajar unos días un fin de semana y

formalmente no da tiempo para retener porque la nómina ya ha salido a las entidades bancarias para que sea pagada en el mes que corresponde por lo tanto aparece

salta y se comunica y por qué sabemos que se producen cobros indebidos

pues son efectivamente los sistemas de control que ha establecido lanbide los que permiten cruzar miles de datos todos los meses con otros organismos e instituciones y los que desvelan cambios en los expedientes que conllevan asignaciones económicas diferentes hay control en lanbide señor maneiro los mismos sistemas de control que permiten que cada mes

cada vez que aparece una noticia relacionada con el descubrimiento bien por la ertzaintza en colaboración con lanbide bien por lanbide de situaciones de fraude solo se pone el foco en el fraude no

quizá sea que eso no interesa lanbide detecta cada mes cuando realiza todo el proceso de cruces

de cobros indebidos de un total de sesenta y cinco mil nóminas aproximadamente los procesos de reintegro de esas cantidades

lo he dicho antes las diputaciones forales ejercían la misma tarea de control

una carga insuperable para las personas perceptoras el problema de lanbide es que no tenía diseñados dada las dificultades de implantación de lanbide

un procedimiento de reintegro ni tampoco los diseños informáticos necesarios cosa que no es anormal

en un servicio que se implanta prácticamente ex novo

ante este panorama tomamos dos decisiones la primera empezar a dotarnos de esos instrumentos a los que he hecho referencia tarea nada fácil

que nos permitirá dotarnos de una plantilla estable para el desarrollo de esas tareas

ha sido largo no ha concluido y todavía no disponemos

la segunda importante en cualquier caso priorizar sin ninguna duda la tramitación y resolución de los nuevos expedientes

mire señor maneiro si tengo que elegir entre demorarme en recuperar un cobro indebido que tarde o temprano se realizará

para cobrar una prestación que necesita para vivir yo no tengo duda esta es mi prioridad otorgar las prestaciones a las personas no las que se la merecen sino que tienen derecho a ellas

que no es nuestra mayor preocupación que haya un alto volumen de cobros indebidos pendientes de reintegro esto no quiere decir que no nos preocupe con que hubiera

nos preocuparía porque es dinero público señor maneiro y somos muy respetuosos con la gestión del dinero público por cierto yo de su intervención

es que cobremos las cantidades indebidamente pagadas o que no lo hagamos

apuesto por que esas cantidades vuelvan al seno del gobierno sabemos dónde están los problemas y pronto vamos a empezar a recuperarlos estamos ya en ello de forma sistemática y eficaz y sin dejar a nadie en situación de desamparo por cierto señor maneiro

no una notificación una información y las personas todas y cada una conocen y tienen una resolución de lanbide

cuál es el origen de ese cobro indebido nada más muchas gracias eskerrik asko

sí señor consejero le he visto muy a la defensiva

a veces bajamos a la tribuna para preguntar al gobierno qué es exactamente lo que ha pasado

y qué es lo que va a hacer en el futuro eso es lo que he hecho yo

he bajado para preguntar y estaba dispuesto a escuchar

excesivamente a la defensiva yo lo que básicamente quería es escuchar al gobierno

los errores que se han podido cometer cómo piensa subsanarlos los problemas que han existido y que siguen existiendo y qué es exactamente lo que va a hacer en el futuro para que no vuelvan a suceder estos problemas o al menos minimizarlos yo no he dicho que las cartas fueran una notificación lo ha dicho

yo he dicho que era una comunicación informativa creo que ha sido así efectivamente porque además usted lo ha señalado en la respuesta anterior y he tomado nota y efectivamente es una comunicación

yo creo que he sido bastante moderado he hablado de escándalo y de chapuza monumental sí pero porque estamos hablando de cincuenta y seis millónes de euros que tiene que

que evidencia que alguien se ha equivocado durante los últimos meses porque además este hecho afecta directamente a los ciudadanos que peor lo están pasando

a nosotros es decir la preocupación por esos ciudadanos y preguntar al gobierno sobre qué es lo que va a hacer en relación a esta cuestión en el futuro y pedir por lo tanto responsabilidades

y habla de programas informáticos que son erróneos o que o que son mejorables habla de procedimientos que no son perfectos y habla de

que se mejore además dice usted que la mayor parte de los cobros indebidos se generan porque hay una modificación

condiciones y que no siempre es consecuencia de la mala gestión de lanbide bien sea por lo que sea lo cierto es que se producen cobros indebidos o pagos indebidos y yo creo que lo mejor es limitar al máximo esos pagos

para que luego no tengan que recuperar o devolver mejor dicho esos dineros a las arcas públicas por eso sobre todo por eso hay que reducir esos pagos indebidos yo evidentemente aquí no he hablado en ningún caso de fraude

creo que no estamos aquí hablando de fraude estamos hablando de errores de mala gestión que debe ser corregida en fin y esto es lo que nosotros preguntábamos y esto es lo que nosotros nos preocupaba

efectivamente se tienen que introducir mejoras que existen problemas que se van a solucionar están ustedes trabajando en ello eso es lo que nosotros queremos que el gobierno corrija todos los errores haga que lanbide funcione de la mejor manera posible

perfectamente a todos los ciudadanos que tienen derecho a cobrar esas ayudas sociales que se les informe perfectamente bien que nadie quede sin las ayudas que necesitan y evidentemente

errores y todas estas incomodidades que están sufriendo miles

muchos errores señor consejero uno de cada seis son cincuenta y seis millónes de euros yo creo que son muchos errores que el gobierno tiene que corregir

nuestra opinión es que ustedes tienen que corregir cuanto antes este error

venía a decir preguntarle escucharle y vigilar en definitiva la acción del gobierno eskerrik asko maneiro jauna erantzuteko aburto jauna zurea da hitza

lo está corrigiendo y lo vamos a seguir corrigiendo nada de lo que he contado antes es nuevo para esta cámara hemos iniciado el cumplimiento de un compromiso que adquirimos aquí mismo

a petición del partido socialista dije que el plan de trabajo definitivo en el mes de mayo de dos mil trece basado en la priorización de asuntos a tramitar

demorando indirectamente el plazo de resolución de asuntos no prioritarios e incrementando

los cobros indebidos así lo dije usted asistió aquella comisión el once de ese mismo mes de diciembre de dos mil trece dimos cuenta de cuál era la cuantía de los cobros indebidos
el siete de mayo de dos mil catorce dijimos que no existía isiltasuna

la mejora de la gestión de lanbide creemos que es notoria anunciamos que habíamos implementado medios informáticos necesarios para detección de irregularidades

todo eso hemos venido haciendo en lanbide el propio ararteko ha reconocido que nuestras comunicaciones

pero mire para que alguna otra parlamentaria también lo escuche nosotros no actuamos a reacción de nadie sino en ejercicio de nuestra responsabilidad en el mes de marzo

un proceso piloto cogimos mil expediente hicimos todo el procedimiento

con notificación motivación y alegaciones el noventa y dos coma cinco por ciento de los casos

pagaron sin ninguna alegación el siete coma cinco por ciento hicieron alegaciones ante esta realidad entendimos que

enormemente costoso como usted sabe y mucho más caro también señor maneiro si hay posibilidad

cuál es la razón de ese pago indebido o de ese cobro indebido tienen el justificante y si ahora les comunica que tienen posibilidad de hacer ese pago y lo pueden hacer en plazos con pago único o con compensaciones en nómina de esas tres maneras

quizá entendemos que de una manera voluntaria podemos empezar a recuperar esas cantidades

dimos ese paso enviamos las diez mil cartas ya he dicho que quizá no era correcto enviar todas a la vez y hoy una semana y media después podemos dar algunos datos la gente a veces no es como pensamos

como esa entrevista o ese caso que aparece en determinado periódico

interesan menos mire en solo unos días trescientos cinco casos de pagos únicos directos en el banco abonándose ciento sesenta y uno mil ochocientos nueve coma veinticuatro euros además en nómina o fraccionamientos solicitud de fraccionamientos

a día de ayer otras setecientos veintisiete caso es decir en total mil treinta y dos y de estos setecientos veintisiete el montante económico

es decir señor maneiro mil treinta y dos expedientes que ya nos han dicho que están de acuerdo que quieren pagar algunos lo han hechos otros dicen que se descompensen en nómina y otros han establecido un pago fraccionado es decir

es decir el cinco coma treinta y dos por ciento del montante económico yo señor maneiro creo que merece la pena yo creo que

y yo creo que si lo podemos hacer de forma voluntaria mejor que mejor y

al procedimiento administrativo en los casos en los que no se produzca el pago voluntario estos son datos de ayer hoy seguramente los datos serán diferentes y mejores

que el sistema funciona es responsabilidad de todos señor maneiro eskerrik asko aburto jauna gai zerrendako hemeretzigarren puntua interpelazioa

presidenta señorías señor gatzagaetxebarria

sobre el empleo estamos seguros de compartir con usted una enorme preocupación por la evolución del empleo en el país vasco

no solamente con la preocupación sino también con las soluciones sabe que el partido socialista desde una responsabilidad limitada y menor que la de ustedes

tender la mano y sabe sumar para tratar de poner soluciones al problema del empleo y precisamente por esto porque estamos comprometidos porque damos pasos

en esta cámara a hacer política en acuerdos políticos y hacer política en los presupuestos por eso queremos

tratar este gran problema sobre todo al calor de algunas cosas que están pasando últimamente

aproximadamente tres cuatro meses junio julio agosto septiembre en una incertidumbre total sobre la evolución de la economía en una incertidumbre total sobre la evolución del empleo y además en distintos momentos en los que

menos de treinta días lo mismo se dan previsiones buenas que se dan previsiones más moderadas que se dan previsiones más pesimistas

primero para dar señales de que un gobierno hace algo en relación a este problema es gravísimo para estimular la economía que es absolutamente imprescindible es gravísimo para generar confianza

es por lo que algunos datos son inapelables es inapelable que por encima de que en agosto

o que en septiembre haya habido una cifra diferente es inapelable que tenemos una bolsa de ciento setenta mil parados en euskadi

cronificándose que podrá tener algunas variaciones hacia arriba y hacia abajo

un problema tremendo que pasa de ser algo

estructural o de ser algo coyuntural a ser

estructural y por lo tanto tenemos la obligación de revisar qué está pasando qué estamos haciendo

activa de este gobierno con los impulsos y con los apoyos que sean necesarios pero una política que de verdad genere economía genere riqueza genere

mire en estos momentos la situación es tremenda el año dos mil trece se cerró y el año dos mil catorce se inauguró

sobre todo del gobierno de españa pero con una propaganda infame sobre la recuperación

lo que pasa es que era muy difícil ponerse en contra porque era como ser excesivamente agorero pero efectivamente

apreciar de verdad en términos sociales no en términos publicitarios lo que es la recuperación de la economía y lo que es la recuperación del empleo y en estos momentos se está demostrando todo esto está bastante desbaratara ya esa propaganda

usted sabe que los últimos meses las últimas semanas lo que es política económica y política de empleo

por fracasos el banco central europeo recientemente puso una cantidad importantísima de dinero a disposición del crédito a un coste pequeñísimo y como ya se relató y se publicó ha sido un fracaso porque no se piden créditos no se piden créditos porque no hay signos de recuperación de la economía porque no hay actividad económica

inversión que se podría hacer por emprendedores si realmente hubiera posibilidades económicas usted sabe que el consumo

usted sabe que lo que nos rodea y sabe que nuestro primer cliente como vascos es españa nuestro segundo cliente es francia

y como está el consumo y como está la economía en francia francia aplicando recortes y españa en un plan de estabilidad del que se habla poco de aquí al año dos mil diecisiete en el que con la unión europea se ha comprometido hacer recortes de todo tipo y usted sabe que eso

generales del estado más allá de lo que diga el señor montoro que tiene una gran habilidad para decir lo que no es verdad más allá de eso usted sabe que los presupuestos generales del estado

cifras y de situaciones estamos no hay elementos que en estos momentos estimulen la economía

que vaya haber en los meses siguientes ninguna iniciativa económica privada que vaya a estimular esa economía estamos en dientes de sierra unas veces más cerca y otras veces más lejos

a la deflación estamos en una situación francamente

algunos se conforman con que estemos planeando sobre el suelo al que hemos llegado es decir que algunos creen que como es difícil ya bajar más mientras estemos ahí mientras hayamos tocado suelo y mientras nos arrastremos por ese suelo

obviamente a los que llevan cinco años cuatro años tres años dos años un año en el desempleo no les consuela nada y al estímulo de la economía hacia el futuro tampoco por lo tanto

empezando o siguiendo por donde he empezado estamos preocupados estoy seguro que compartimos

pero no es suficiente con que estemos preocupados ustedes son el gobierno y gestiona una buena parte de los recursos del conjunto de la ciudadanía instrumentos tiene recursos para poder hacer políticas activas de empleo y además nosotros se las hemos facilitado nosotros

a conseguir vencer sus resistencias y las de algunos más

a las haciendas públicas y también a este gobierno nosotros con nuestro compromiso con la ciudadanía hicimos un acuerdo político ya hace un año ha pasado más de un año

compromiso político aquel acuerdo político que sobre todo reflejaba una preocupación por el empleo y medidas para hacer empleo hablaba de planes de empleo hablaba de políticas de empleo

para el año dos mil catorce que había que poner en marcha los presupuestos sino para toda la legislatura se planteaban objetivos de empleo nosotros en nuestro compromiso con la ciudadanía y en nuestra responsabilidad por dar soluciones a los problemas del país por ser útiles a los ciudadanos y ciudadanas vascas

y que se consignara ese acuerdo político y esa política fiscal reformada en esos presupuestos sin embargo no terminamos de ver el plan de choque de este gobierno

que queremos ser parte de él que somos parte activa que estamos comprometidos con él y que por lo tanto no estamos montados en la crítica en la persecución

de dónde están los errores o las insuficiencias de este gobierno eso ya se refleja desgraciadamente en las cifras oficiales eso está reflejado en la realidad social del país nosotros venimos a esta sesión de control e interpelamos de esta manera porque es sumar para avanzar sumar para arreglar para mejorar y yo espero que usted tenga algo que decirnos al respecto usted inició este año con unas previsiones e incluso muy recientemente

a primeros de agosto otras a finales de agosto otras en septiembre usted y miembros de su partido entre ellos el lehendakari o responsables políticos del partido nacionalista vasco unas veces estamos bien otras mal unas veces el otoño va a ser dulce otras veces el otoño va a ser catastrófico bueno

en esta cámara a decirnos algo más a decir a la sociedad no solo ya al grupo socialista que en este caso actuamos como intermediario de la sociedad están obligados a decir a la ciudadanía vasca qué están haciendo con el empleo qué están haciendo con los instrumentos que les pusimos en la mano qué esperanza hay para ciento setenta mil personas que están paradas

si no hay una reactivación de la economía esta es la interpelación

menos recursos en relación con los años once

el cuadro macroeconómico del ejercicio dos mil catorce se acuerda usted de la previsión del gobierno

y un crecimiento del producto interior bruto en términos reales inferior un poco inferior al uno por ciento actualizamos el cuadro macroeconómico con qué para qué

el presupuesto del año dos mil quince se acuerda usted de lo que decía en las directrices ahí hay una contradicción en ese discurso parece como que hay ambivalencia no no crecimiento del uno por ciento

el año dos mil catorce no se creará empleo ese mismo escenario es el que hoy se mantiene y que yo tuve

que estamos en este momento pues elaborando los presupuestos y tienen que ir

del segundo trimestre de la economía vasca es una dato muy importante que a este se le ha olvidado y analícelo usted con el cuadro macroeconómico del mes de mayo las directrices

espantoso que nosotros teníamos una previsión para el segundo

de la economía vasca de que se seguía destruyendo empleo en ese trimestre y qué ha ocurrido me imagino que usted lo tiene que saber

qué ha ocurrido que ha dado un crecimiento de empleo mínimo muy mínimo en fin no vamos a poner énfasis en eso de un cero uno es mejor eso que lo contrario

que no hacer un discurso eufórico un discurso que no tiene un

un soporte en la economía real y eso quiere decir que hay una parte del año donde efectivamente

pero hay una parte del año y ya no es una previsión o una afirmación mía es estadística oficial con cuentas económicas de que el segundo trimestre del año dos mil catorce

en el conjunto del año como arrastramos un período importantísimo de destrucción de empleo medido como hay que medir en cuentas económicas ya sé que hay otros agentes que utilizan otros

del diseño de las cuentas económicas y de la medición esta va a ser la posición oficial del gobierno el empleo se mide en cuentas económicas

bien a eso qué se le añade tenemos un contexto económico en el que en el mes de agosto han pasado cosas importantes

una de las muchas cosas que hemos podido leer en estos días

el gobierno vasco no oculta su satisfacción por una recuperación económica que le va a permitir elaborar unos presupuestos para el dos mil quince diferentes

ya ha pasado unas cuentas en las que no tenga que preguntarse de dónde recortar sino más bien

aunque le ha tocado la previsión de crecimiento del producto interior bruto vasco para este año fijada por ciento ha elevado hasta el uno coma siete por ciento la del dos mil quince mire son noticias yo tampoco le voy a dar más importancia a veces son sensaciones o declaraciones que uno hace

las interpelaciones de las preguntas o de los reflejos de prensa pero es parte de lo que llega a la sociedad como literatura de la política

elementos concretos de política a favor de la economía

yo creo que la política está sobrada de declaraciones y su gobierno está sobrado de declaraciones pero está falto de concreciones está falto de materialización de políticas

con frecuencia viene aquí y intenta utilizar un planteamiento de carácter didáctico sobre las cosas y nos explica de dónde viene una cosa de dónde vienen otra no no es esa su función

los plenos de control o por lo menos las iniciativas que nosotros presentamos aquí como un trámite en el que hay que acabar con diez minutos y cuatro más de réplica o de menos cuando son las preguntas no no usted

que ilustrar con datos usted tiene que aplicar soluciones usted tiene que resolver los problemas usted no está aquí para hacer didáctica

y por eso le tenemos que exigir mucho más de lo que explica en esta tribuna usted nos dice que en agosto mejor dicho en septiembre porque lo de agosto le he dicho yo

y lo suma los dos el balance es negativo pero yo no voy a entrar en eso porque son datos muy concretos el problema no son los datos de agosto y de septiembre

es que este es el problema el problema es que la economía vasca no tira en su conjunto y como no tira no puede resolver eso y por el paro podrán ir rotando unos y otros trabajadores y no voy a hablar además de los contratos porque hoy lo ha hecho la unión general de trabajadores y ha dicho

empleo precario por lo tanto ya veremos qué pasa mire voy a explicar a usted que ya lo sabe por qué en agosto

un descenso del empleo en las circunstancias en las que estamos y en septiembre un aumento

en que haya desempleo o que haya paro pero esto no es el fondo del asunto

una cifra concreta pero no es el fondo del asunto el fondo del asunto es qué está haciendo este gobierno para tratar de resolver problema crónico del paro cuando nosotros hicimos un acuerdo con ustedes el año pasado y cuando facilitamos que se hicieran los presupuestos no lo hicimos pensando en las cifras que podría haber en el mes de agosto y en el mes de septiembre

si la memoria económica de sus presupuestos hablaba de un crecimiento del uno del uno coma dos y luego bajó o si hablaba de moderación

nos pusimos de acuerdo para llevar adelante un plan de choque entienda esto es un plan de choque

es un plan de choque para un desempleo es un plan de choque es que este gobierno instrumentos es que se los hemos puesto nosotros en la mano es que este gobierno tendría que estar en estos momentos con una velocidad de crucero extraordinaria con aquellos compromisos que hicimos

de los presupuestos pero es que no lo están haciendo es que no reaccionan suficientemente es que van lentos es que van mal el otro día en el pleno de política general el propio lehendakari aceptaba que había retrasos que se podían haber hecho más cosas oiga le estamos diciendo que hagan las cosas y traigan aquí algo más traigan más fundamentos traigan más materias traigan más chicha traigan más esperanza a los parados más esperanza a la economía

que para eso ya tenemos las obras de la tercera edad eskerrik asko prieto jauna erantzuteko

señor prieto ha hecho usted una teatralización muy interesante pero qué son materias y chicha qué concepto económico es eso intelectualmente

oiga a qué juega usted traiga usted materia y chicha aquí

vacío de contenido conjunto vacío eso es lo que se llama en el juego intelectual ha hecho usted un conjunto vacío por lo tanto si ha hecho conjunto vacío pues en sus propios términos queda calificado su propia intervención pero mire infiriendo a lo serio porque como

al fondo del asunto oye el gobierno está gobernando y está gobernando

la obligación de hacerlo yo tengo el deber de responderle a usted le he dicho pero

porque usted cuando sabe cita el periódico la fuente y el autor pero cuando no sabe dice que es una noticia que dice que está a qué jugamos nuevamente conjunto

vacío no mire vamos a ir a fondo del asunto coincido con usted en que es necesario

si hay una estrategia de reactivación económica y empleo

que tiene dos segmentos importantes o dos columnas importantes

el tema de la innovación del desarrollo tecnológico en una estrategia que se aprobará dentro de unos meses la inversión

de octubre del año pasado conoce usted el volumen de inversión que hay en los presupuestos de la comunidad autónoma

del segundo soporte de la acción política del gobierno era el empleo si le he dicho

y además emana de un acuerdo que suscribimos con usted por cierto un buen acuerdo y que

está desarrollando todas las acciones necesarias porque no puede olvidar una cosa y la responsabilidad es lo que hace decir también y le reitero en una situación de menores recurso ordinarios en mayor demanda de servicios y estamos haciendo dos cosas

política de cohesión social con políticas de desarrollo y de avance en el país

el potencial económico de este país son dos la competitividad de la economía vasca sustentada en las personas en la formación

capacidad de adicionar valor añadido a nuestro sistema productivo de bienes y servicios y tenemos un tejido tecnológico en innovación y en desarrollo en las empresas medianas y en las pequeñas pero más en las medianas y grandes también que nos da ese elemento de competitividad ese es un elemento principal y estamos cohonestando las dos políticas

cuando se necesita y enlazo con un debate que ha habido hace unos minutos mayores recursos para satisfacer un derecho público subjetivo como es la renta de garantía lo ha dicho bien antes el lehendakari el gobierno pone los esfuerzos en eso y debemos

que esta cámara ha dejado como privilegiado que en cualquier situación y efectivamente los recursos siempre son limitados hay un crédito privilegiado presupuestario en el gasto que es

de las personas que están en exclusión social a cobrar la ayuda establecida por esta cámara y eso es así porque lo ha establecido este parlamento por eso estamos haciendo

le reitero la senda evoluciona favorablemente claro pero es una senda como yo decía la semana pasada con un crecimiento de la economía moderado

algunos otros agentes utilizan elementos de comunicación pública o política

de euforia no es nuestro estilo el rigor nos ha dado la razón

pensábamos que íbamos a producir destrucción de empleo y minimamente sea producido no podemos hablar que un cero coma uno sea una producción

vamos a dejarlo en que no se ha destruido y así lo vemos

pero estamos actuando y fíjese como han variado las cosas de decaer en negatasas negativas el año dos mil doce un dos por ciento en el producto interior bruto a caer un uno coma dos con la actualización del nuevo sistema

a la previsión de este año que estamos creciendo y no para de crecer la economía vasca desde el último trimestre del año dos mil trece y esperamos terminar la senda de crecimiento en este año

con esa acción pretenden chantajear al gobierno digo yo no sé

en nuestras manos poder utilizar ese edificio para impartir educación primaria estamos dispuestos a seguir trabajando para que el obispado y el ayuntamiento lleguen a un acuerdo porque le recuerdo que nuestra propuesta de escolarizarles en otro local del municipio ha sido rechazada por las familias ezin dugu legalki

el once de septiembre por vía de la viceconsejera de educación envió una comunicación difícil de caracterizar a los centros educativos de primaria

parecía introducir unas orientaciones como le digo es un género en la comunicación difícil de caracterizar unas orientaciones para primero tercero y quinto de primaria pero que al mismo tiempo decían incluir

realmente nos mantiene en una confusión en una ambigüedad tremenda si usted está aplicando o no aplicando

de esos valores sociales y cívicos es una reproducción exacta de la norma del ministerio salvo en una cosa salvo en la realidad

la pregunta es hoy es criterio del gobierno impregnar los currículos del proyecto heziberri dos mil veinte que también orienta

de la comunicación remitida a los centros educativos por la viceconsejera de educación nada más y muchas gracias eskerrik asko celaá andrea erantzuteko uriarte andrea zurea da hitza

izan da además se indica claramente que estos contenidos se incluyen a modo orientativo de manera transitoria en términos abiertos

en consecuencia son los propios centros quienes de manera transitoria establecerán los contenidos específicos en función de sus proyectos curriculares

hasta la publicación de la propuesta curricular definitiva junto con el nuevo decreto de educación primaria y secundaria

ante una propuesta previa al documento definitivo en el que venimos trabajando con la comunidad educativa desde hace tiempo eskerrik asko uriarte andrea

señora consejera es usted consciente del conocimiento que hoy comparten los centros educativos sus profesionales de educación

interinidad provisionalidad y seguridad jurídica con la que la educación se está desarrollando en esta comunidad usted lleva dos años y la educación es

con la ciudadanía usted manda once de septiembre

unas llamadas orientaciones que no sabemos que carácter tienen no sabemos no hemos conocido eso nunca orientaciones a los centros educativos

las pasamos con consulta y que contienen desde luego determinadas cuestiones que pondrían reproducir lo que fuera la educación para la ciudadanía querida por nosotros pero que desde luego la introducción reproduce exactamente la introducción al área exactamente la lomce con una exclusión

porque la educación tiene que transmitir la verdad y la verdad institucional también es decir la escuela pública y la educación pública tiene que ser acogedora absolutamente de todas las ideologías y las ideologías se dejan fuera se dejan en casa se deja para este

mire usted señora usted no puede coger y hacer tabla rasa de nuestra realidad institucional no es de recibo que estas instrucciones orientaciones para usted

en educación para la ciudadanía de primaria conocer asumir y valorar los derechos y obligaciones que se derivan de la declaración universal de derechos humanos de la convención sobre los derechos del niño

que sirven para valorar éticamente las conductas personales y colectivas esto para usted no es disponible no es disponible para este gobierno este gobierno

tiene que comunicar esto en todas las escuelas de euskadi esta es la realidad institucional y ningún otro ideario ideológico por legítimo que sea

ni sustituirla por lo tanto yo le digo si esto es una introducción a la materia haga usted el favor de introducir los valores constitucionales en la materia porque esta es nuestra realidad institucional

la preparación de las alumnas y los alumnos para actuar como ciudadanos y ciudadanas

la defensa y el desarrollo de la sociedad democrática el objetivo del área tal y como lo planteamos es orientar al alumnado para comprender la realidad social

respetar los valores universales crear un sistema de valores propios y participar activamente en la vida cívica de forma pacifica y democrática en definitiva

ofreciendo unas orientaciones que le sirva de ayuda para concretar los contenidos curriculares de esta asignatura

a todos los pacientes que lo precisan doy por formulada la respuesta eskerrik asko darpón jauna

con otro medicamento que forma parte de esta nueva generación y que ya se ha empezado

contradiciendo de esta manera lo que algunos expertos en la materia aseguran porque dicen que este medicamento es capaz de revertir en cuestión de semanas

sorprenden sus palabras y se contradice porque si tuviera tantas dudas no lo estarían aplicando hilabete batean zehar jakin dugu osasun sailaren iritzia tantaz tanta ezer

penagarria lotsagarria iruditzen zaigu a estos pacientes les ha dado esperanzas esperanzas de vida

hay que tener gallardía para afirmar que se está haciendo propaganda con este medicamento cuando aquí los únicos que han hecho propaganda con este tema han sido ustedes propaganda que no ha contribuido más que a confundir a estas enfermas y enfermos personas que tocan la puerta de su consejería buscando una respuesta personas a las que ignoran hubiera sido mucho más elegante y aclaratorio por su parte que hubiese compadecido a petición propia en este parlamento para explicar a qué pacientes se lo va a suministrar en lugar

y enfermas más que a abocarles a una situación de angustiosa incertidumbre esperaremos a que responda a nuestra solicitud de comparecencia y tendremos ocasión de escucharle

zuretzat nortzuk dira gaixo larriak las personas que han pasado por un

animan a que sigan luchando no necesitan palmaditas en la espalda necesitan curarse necesitan que hoy sea usted claro y mientras tanto los médicos

para sus pacientes les animan afirmando que van a recibir el medicamento y no les llega qué duro no les llega y quieren vivir lo han dicho ellos señor darpón le voy a pedir un favor en este segundo turno no me responda a mí no responda a eh bildu conteste a los que llaman a su puerta y no reciben respuesta conteste a los enfermos que esperan

contesteles a ellos porque esperan con ansiedad que usted sea claro eskerrik asko eskerrik asko blanco andrea erantzuteko darpón jauna zurea da hitza

blanco andrea nos ha dado una estupenda clase de demagogia estupenda

veo que sabe poco no lea usted los suplementos las enfermedades no se leen y los tratamientos en los suplementos de los medios de comunicación

a que se le niegue el tratamiento disponible más adecuado

son los médicos los que deciden los tratamientos que reciben los pacientes en el caso concreto de la hepatitis cien los especialistas de digestivo y de enfermedades infecciosas

para los casos más complejos en ningún caso

ni economicistas sino en base a criterios científicos y de legalidad

incorporando fármacos que tienen valor añadido y los incorporamos de acuerdo a la ciencia

no cuando salen en el periódico cuando se puede recetar y lo necesitan los pacientes pero eso lo definen los médicos a los pacientes con hepatitis cien se les suministra el tratamiento más adecuado

el estadio de su enfermedad la respuesta a los tratamientos previos y la gravedad del daño hepático además si ha leído usted los periódicos verá como hasta el próximo uno de noviembre el medicamento sofosbuvir no cuenta con la autorización preceptiva

salvo para uso compasivo una fórmula excepcional para los casos más graves que es lo que estamos haciendo bajo esas condiciones se prescribe desde julio somos la comunidad que primero empezamos a tratarlo bajo uso compasiva y la que más pacientes tiene tratados

por mucho que diga usted no es un medicamento milagro no es igual de efectivo para todos los paciente

muy concretas afirma usted categóricamente a la pregunta además que hasta hace poco esta enfermedad viene incurable pero a dónde vamos

infórmese bien y no haga demagogia política con un asunto tan serio las multinacionales farmacéuticas efectivamente tienen sus intereses y sus estrategias comerciales no pensé yo que su grupo se iba a alinear con ellas pero tenga en cuenta que los intereses de las

ni con los de los sistemas universales de salud como el nuestro la ciencia avanza día a día día a día

pasa todos los meses y desde hace más de treinta años hemos incorporado los medicamentos

a los paciente que los necesitan tratamendu egokienak

plenaria vamos a hablar de foronda vamos a hablar del proyecto viap polígono

aeropuerto y vamos a hablar sobre la base de lo que el gobierno vasco prevé

nuevo parque empresarial a pie de pista en vitoria el aeropuerto de foronda especializado en carga área evoluciona como nodos de actividad económica productiva especializado fundamentalmente en correo pereceros el aeropuerto vasco de foronda situado a ocho kilómetros de vitoria ocupa el cuarto lugar el gobierno vasco a través de sprilur proyecta dar un paso más

el concepto tradicional de polígono industrial con el de los centros de carga área de los grandes aeropuertos

todos ellos situados en el interior de los recintos aeroportuarios y va y no da el paso y no da el paso porque comunica que no lo da porque sprilur dice que no sprilur tiene un presupuesto para esa inversión de terrenos

que ya lo conocemos todos además el famoso consejo vasco de promoción económica el pasado diecinueve de noviembre de dos mil trece afirmaba en relación con las inversiones previstas

todos conocen en relación con esta cuestión y no será además por protocolos por convenios por acuerdos por

ha anunciado la paralización de las actuaciones en relación con el proyecto

no se haya anunciado que no de más explicaciones

departamento ha dado y le preguntamos qué instrucciones ha dado a su departamento si no es el suyo el gobierno vasco

cuestión en relación con la paralización de las previsiones contenidas en presupuestos

todos queremos lo mejor para foronda y el gobierno vasco es el que tiene fundamental capacidad para liderar este tema muchas gracias

se caracteriza por dos hechos básicos ambos negativos en primer lugar el desmantelamiento de sus fortalezas competitivas esto es el veinticuatro horas

la fuerte competencia que su propio titular aena somete al aeropuerto potenciando otros próximos o incluso creando otros como burgos o vigo en este contexto cierto es que existen convenios varios entre

de los que dimanan acuerdos y compromisos para cada una de las partes no puedo detenerme en todos ellos pero aludiré al que usted se refiere en su propio escrito y que además es clave en este proceso

de cooperación y colaboración para el desarrollo conjunto del polígono

urbanística y sectorial del proyecto sin la que el resto es imposible la redefinición y modificación del plan director y del plan especial aeroportuario a la que se obligó por ser la titular del aeropuerto la única que puede abordar

y que debe ser primero de todos los demás pues bien casi cuatro años más tarde nada sabemos por eso incurre usted en una contradicción en su escrito de pregunta

por el que se aprueba el plan director del aeropuerto de vitoria bien señor barrio

la modificación de esa orden a la que se le obligo aena hace casi cuatro años porque bien sabe que sin ella

no ya de materializar sino de tramitar eskerrik asko oregi andrea barrio jauna zurea da hitza

señora consejera no me hable de otros háblemede ustedes que ustedes pueden

porque se pusieron precisamente a la cabeza de la cuestión en negro sobre blanco a la hora de actuar

es decir si ustedes de verdad quisieran fomentar foronda lo habrían hecho habrían empezado habrían liderado conversaciones

y no se escude en otras cuestiones no se escude en el tema veinticuatro horas ni en los otros temas porque sabe usted que no es verdad sabe usted que ese tema

deben liderar ustedes la reordenación de los vuelos en la comunidad autónoma vasca para que foronda tenga más capacidad para que foronda gane esas veinticuatro horas es decir ustedes se esconden detrás de reglamentismos de formulismos pero ustedes no cumplen los convenios y ustedes no hacen lo que tienen que hacer la diputación foral de álava en los convenios que firmó con sprilur

son ustedes señora consejera los que no están cumpliendo son ustedes los que están dejando foronda atrás y en ese sentido no se escude en otras cuestiones lidere y si hay que redimensionar redimensione pero también lidere usted
la capacidad de negociación de acuerdo y de diálogo y de acercar las partes muchas gracias eskerrik asko barrio jauna eta

clave para la articulación y desarrollo de un sistema logístico vasco integrado dos el gobierno vasco mantiene firmes

que reitero requiere de la previa insoslayable redefinición y modificación del plan director y del plan especial aeroportuario a realizar y tramitar

o bien se han cumplido o bien se encuentran pendientes de las modificaciones por aena de los citados plan director y plan especial aeroportuario sin embargo señor barrio

foronda su futuro depende principalmente de la voluntad institucional para concertar ese futuro usted y yo u otros que vendrán después podremos enzarzarnos en las fáciles discusiones de tú más

que el tiempo que no aprovechemos será tiempo perdido y hará ruina en las paredes de foronda